gracias presidenta hoy no me voy a exaltar en la contestación como

veintinueve de octubre en el pleno porque llego a la conclusión de

es que ustedes no escuchan no escuchan lo que se dice en la tribuna por los demás

en este caso adoptaron la decisión de prohibir las aportaciones por las administraciones públicas a los sistemas de previsión social voluntaria desde el año dos mil doce tienen una obsesión que ya de tanto escucharla suena un poco a cachondeo y es que hace su gobierno

que hayan hecho otros para echarle la culpa del recorte que han realizado ustedes a otro ustedes durante cuatro años han castigado con sus políticas a los funcionarios y hasta las puertas de unas elecciones no se han acordado de ellos otra vez esa es la realidad y cuando pasen las elecciones ya veremos lo que vuelven a preocuparles otra vez este colectivo lo que espero no obstante

sino que sea el grupo socialista el que lo decida con posterioridad no han hecho las ganas que tienen de que salga su moción es tal que ni siquiera han llamado por lo menos a mi grupo

para intentar acordar esas son las ganas que tienen de acordar con el resto de grupos parlamentarios que salga su enmienda lo único que quieren es lavar la cara en esta tribuna porque si no lo hubieran intentado

a nadie a nadie pero bueno ustedes simplemente querían hacer hoy un postureo yo le digo en el tema de presupuestos el otro día no me escuchó lo que yo dije el otro día es que se tienen que sentar a negociar con los representantes de los trabajadores del gobierno vasco

es que hay una paga adelantada es que solo queda cuando paguen el veinticinco por ciento para pagar el cincuenta por ciento de la de diciembre y qué pasa si deciden que en diciembre dejan de adelantar y solo pagan el cincuenta por ciento pues a lo mejor hasta sobra dinero es que se puede dar el caso que se está pagando por adelantado

se podría dar ese caso tienen que decidir cuándo se deja de pagar ese adelanto y cómo se paga el cincuenta por ciento

es que esa es la realidad de la situación que hay esa es la realidad porque se ha cobrado una por adelantado y siguen sin darse cuenta de la situación cómo no va a ser necesario

que es necesario y estoy de acuerdo con el grupo eh bildu que de todas formas con lo que ya aprobamos el otro día

que se produjeron con respecto al tema que viene hoy

el otro día porque de ese decía asimismo negociará con los sindicatos la recuperación de aquellas condiciones laborales perdidas y del empleo destruido durante estos años

con lo cual salga o no salga hoy la enmienda presentada por nosotros

de querer seguir insistiendo en algo que es necesario y es

negocien con la representación social porque es importante porque la situación que hay ahora mismo es compleja y en este momento tan complejo es mucho más importante que nunca a negociar con los sindicatos pero también he dicho que es importante que se defina exactamente si se pasa o no se pasa de la masa salarial la clave está

entonces hay que cumplir lo que dice la ley no se pasa pues entonces a lo mejor hay un margen para empezar a reanudar las aportaciones voluntarias pero no han demostrado

con ningún informe con nada o sea no se sabe realmente si no se cumple o si hay margen

oiga si usted está diciendo es que me paso vale haga el informe

y si se ve en ese informe que hay un margen vuélvase a reanudar se está cumpliendo la ley al haber ese margen y puede hacerse esa aportación durante el año dos mil dieciséis eso es lo serio y eso es lo que aquí nosotros hemos defendido y por tanto lo que mi grupo parlamentario el grupo socialistas vascos va a defender hoy es su enmienda porque sigue

la situación es compleja siéntense a negociar con los sindicatos porque es importante ya sé que ustedes no le dan importancia a la negociación colectiva porque se lo han cargado y a la negociación con los sindicatos porque se lo han cargado durante esos cuatro años o han intentado cargárselo al máximo pero nosotros sí mi grupo parlamentario sí da importancia a esa negociación

porque la situación que han creado ustedes es muy compleja y eso se tiene que hacer acordada con los sindicatos de esa forma será

afectados por todos sus recortes nada más y muchas gracias y por tanto les pido el apoyo

a la enmienda presentada por el grupo socialista perdón y a bildu que se me había olvidado apoyaron nuestra enmienda transaccional porque la firmamos juntos

nuestra enmienda hoy es prácticamente lo mismo que el punto tres que aprobamos
el otro día pues les pido su apoyo porque es exactamente igual prácticamente de lo que aprobamos el otro día nada más y muchas gracias eskerrik asko sánchez anderea

vamos a defender nuestra enmienda porque anteponemos la seguridad jurídica

encima de la mesa la seguridad jurídica no es algo que es baladí están en juego

de empleados públicos en esa línea pedimos al gobierno que siga trabajando siga trabajando y que siga utilizando todos los recursos que tiene a su alcance tomando en consideración como digo el principio de seguridad jurídica

que mejoren las condiciones laborales de los empleados de la administración general de la comunidad autónoma porque en esta cuestión en mejorar esas condiciones sobre el qué no habrá dudas y se concitarán adhesiones y unanimidades

en esta cámara señor ruiz de arbulo nos corresponde trabajar y llegar a acuerdos en torno al cómo y del cómo no he oído a ningún partido a ningún grupo parlamentario hablar exactamente de cómo podemos llegar a ese cómo cómo podemos llegar a mejorar las condiciones

de los trabajadores de la comunidad autónoma con respecto a lo dicho por bildu

me da que ustedes no son aficionados a las lecturas bíblicas pero aquí creo que es de aplicación en la frase de que por sus hechos

brevemente remitirme a lo hecho en esta materia por la diputación foral de gipuzkoa cuando ustedes gobernaban

mágica la poción mágica o la fórmula por la cual todo el valor

y las brillantes iniciativas se les ocurren siempre cuando están en la oposición respecto a los socialistas lamento profundamente no haber podido llegar a un acuerdo hemos estado hablando sobre

creo que había un terreno común para ese acuerdo

nosotros habíamos mostrado una voluntad de reanudar esas aportaciones siempre fuera posible en el marco legal vigente pero sí me gustaría

subrayar la falta de coherencia del partido socialista que acaba de anunciar a bombo y platillo un acuerdo presupuestario para supuestamente mejorar las cuentas del gobierno urkullu y un día más tarde propone resoluciones directamente contra ese acuerdo creo que es una contradicción evidente y creo que lo ve

de incremento en el capítulo primero del documento presupuestario porque hay un incremento del uno coma ocho por ciento en ese apartado

hay incremento de la masa salarial hay algún interés por saltarse el marco legal vigente por parte del partido socialista

me habría gustado ver un poquito más de rigor o por lo menos un poco de sentido común yo no voy a pedir

pero a un partido con pretendidas aspiraciones de gobierno

ese rigor y ese sentido común porque hay que hacer un repaso breve por la historia y el repaso breve por la historia nos dice que los gobiernos de madrid

señora sánchez si tiene a bien escucharme los gobiernos de madrid

decidieron mediante decretos las bajadas de sueldos las congelaciones salariales la retirada de la paga extra

la prohibición de aportaciones a los planes de pensión a las previsiones

medidas todas ellas que han afectado directamente al poder adquisitivo de los empleados públicos pero el gobierno de urkullu

y tampoco se han impulsado a iniciativa suya es simplemente para recordar algo que creo que deberían tener presente respecto al partido popular lo sorprendente es que obvie o eche por la borda principios tan suyos como la seguridad jurídica y el rigor presupuestario más cuando

a muletillas como la ley se hará cumplir la ley hay que atenerse escrupulosamente a la legalidad parece que invita

muy contundente por cierto del estado que está aprobada por ustedes parece querer someter al gobierno vasco a los recursos del abogado del estado o de su correligionario el delegado del gobierno

de las administraciones públicas usted da a entender que no hay problemas que no hay litigiosidad este sí que es un acto de fe señor ruiz de arbulo

más de treinta conflictos judiciales abiertos con el estado y cuando habla de hacer los deberes en torno al capítulo primero a qué se está refiriendo exactamente se está refiriendo para de alguna forma poder hacer las aportaciones a las epsv

a amortizar plazas en sanidad y en educación ah no

repito si en lugar de una iniciativa estéril isiltasuna quiere buscar soluciones nos tiene a su lado porque si usted está de verdad

hay que adoptar yo estoy dispuesto a aprender el grupo al que represento

un par de cuestiones en esta última intervención primero es curioso que hoy aquí el partido popular se quiera mostrar como el máximo defensor de los trabajadores y las trabajadoras del sector público ppk

edo beste erabiliz al partido socialista dos cuestiones una acordamos en el pleno de finales de octubre y acordamos tres cosas muy concretas de las cuales una ya el partido socialista no la va a cumplir que es el pago de la paga extra que se debe

el punto tres está aceptado no tiene sentido volver a traerlo a volver a decidir no entendemos esa posición no entendemos la posición

en dos semanas firmar un acuerdo de presupuestos que no da pequeño paso ni uno en ese sentido no es que no se acepte o no se respete todo lo que se decidió en esa proposición no de ley es que nada no se da ni el más mínimo paso en esa dirección

seguridad jurídica nos decía cuando

se nos habla siempre de seguridad jurídica no se puede hacer otra cosa y además siempre nos imponen de madrid cuando hay seguridad jurídica

de madrid no hay margen para movernos aquí no es cierto y no solamente no lo compartimos es cierto hay otras posibilidades el comodín de la diputación foral de gipuzkoa es ya

azken orrialdea erakutsi nahi dizuet bertan dio elcano en uno de los aviones

baita ere dio el rostro del navegante

decora uno de los boing setecientos treinta y siete ochocientos de la línea noruega la noticia señala

esta política de imágenes que destacaba o resaltaba a personajes que han desafiado los límites y las normas y han inspirado a terceros y la pregunta que surge es cuando nos toca a nosotros

que pasasen los días meses y años sin que el gobierno vasco retomase los trabajos y pasos que se dieron para liderar la conmemoración

del quinto centenario de la primera vuelta al mundo por el ayuntamiento de getaria y un recuerdo especial a andoni aristi el gobierno de patxi lópez en colaboración con el gobierno de españa a través de ramón jáuregui que estaba en el ministerio de la presidencia

nos tenemos que poner en marcha a todos los niveles institucionales porque creemos sin duda en la gran oportunidad que nos brinda euskadi y a sus ciudadanos lo que otrora fue un gran acontecimiento la primera circunnavegación realizada por un ser humano

la expedición dirigida por fernando de magallanes compuesta por cinco buques y doscientos treinta y cuatro hombres

hacia una nueva ruta en la búsqueda de especies desde sanlucar de barrameda más de tres años después el seis de septiembre de mil quinientos veintidós la nao victoria al mando de elcano

completando la primera vuelta al mundo con un total

el capitán de la nao victoria fue nuestro juan sebastián elcano nacido en getaria

los tripulantes que completaron la vuelta al mundo junto a elcano eran naturales de axeo rodas

nauplia huelva sevilla bayona aquisgrán bilbao

que completaron la vuelta al mundo porque este dato nos indica que la gesta realizada es sin duda alguna una gesta cuya conmemoración debe

a celebrar a una gesta europea que la propia unión europea debe asumir como tal rememorándola y celebrándola como parte común

las guerras han sido constantes en estos últimos quinientos años y es hora de rememorar en este mundo globalizado que los europeos unidos

que posteriormente han dejado sin ninguna duda una huella en los avances de los europeos pero de la humanidad también con europa el quinto centenario de esta vuelta al mundo perfectamente comparable en los días que vivimos a una próxima aproximación de astronautas a otros planetas es indudablemente para getaria

una gran oportunidad de colocarnos en el mapa europeo y mundial

abriendo múltiples posibilidades de desarrollo para el conjunto de los ciudadanos vascos para ello debemos establecer un programa abierto de conmemoraciones

también en otros territorios de varios continentes y como no

lugar de nacimiento de fernando o hernando de magallanes

europar ordezkari giza lekutzeko tenemos tres años de oportunidades para que haciéndolo bien

dispongamos de una ventana abierta para que el mundo al que dimos una vuelta completa nos conozca conozca nuestras capacidades sepa de nuestros productos

en los mares en definitiva tres años en que debemos aprovechar

que seguro nos van a situar en más progreso y oportunidades de empleo a nuestros parados y especialmente para nuestros jóvenes baita ere gure

inbertsioak erakarri eta eskatu behar ditugu pensemos en tres años en los que podemos

costeando por aquellos puertos por los que valientes marinos lo hicieron hace quinientos años esta vez ofertando en nombre de elcano productos como el vino de rioja alavesa

también nuestra sidra con inmejorables conservas de pescado

a una internacionalización que no podemos perder como objetivo

a otros países y será un hecho que si somos capaces de que nos conozcan querrán vernos para que les mostremos nuestros rincones nuestra tierra una ventana para consolidar un turismo que sin masificaciones como corresponde a nuestra orografía

aporte riqueza en el conjunto de euskadi otros lo han entendido así y a uno le da cierta pena que lleguemos tarde pensando que nos queda mucho tiempo aún hasta el papa ha recibido autoridades de la llamada red de ciudades magallánicas también se está trabajando en la inclusión de la ruta magallanes elcano

hay que moverse y trabajar conjuntamente con el resto de los que sienten también ser parte de esta hazaña cada uno a su manera pero aprovechando

que sin duda surgirán y compartiendo iniciativas con las poblaciones y territorios que tuvieron que ver

potenciando así las acciones que se programen hay cuestiones a corregir y una de ellas es que expresando sin duda alguna nuestro reconocimiento a magallanes extendamos el mismo reconocimiento a elcano desde aquí nos duela no lo tiene comencemos por lo tanto nuestro viaje en getaria con elcano participemos con bermeo recordando a juan de acurio contramaestre o piloto de la nao victoria sigamos hasta bilbao con juan de arratia y terminemos el periplo en euskadi con juan de zubileta paje en barakaldo

parando en cueto con el grumete juan de santander visitando en bayona galicia a diego carmena marinero y vasco gómez gallego grumete

con hernando de bustamante barbero y marinero para ir al sur en huelva

despidiéndonos en sevilla del marinero francisco rodríguez y demos al resto de europa con los tripulantes de la nao victoria dos pilotes

francisco albo y miguel de rodas y otros dos marineros griegos manuel sánchez de rodas y nicolás el griego de nauplia

pigafetta sobresaliente y escribidor de viaje y martín yudícibus marino de savona

suman hasta los dieciocho que he querido nombrar como homenaje sí pero para recordar que era

europea estoy convencido que tal como ellos lo hicieron

y que hoy en esta cámara esto comienza bien con una enmienda transada que recoge los puntos importantes de conclusión que no es más que tareas para abrir de verdad esa ventana que nos brinda el quinto centenario tareas que desde el ayuntamiento de getaria la diputación de gipuzkoa y el gobierno acometerán

en colaboración con todos también con el gobierno de españa para que los vascos que aquí habiten dentro de cien años puedan decir con orgullo lan ederra

por aquellos que hace cien años plantearon una conmemoración que supuso mucho para el desarrollo del pueblo y de gipuzkoa

valor universal que al mismo tiempo refleja la importancia internacional que tenían los vascos a comienzos del siglo dieciséis en la navegación marítima

es más la culminación de la expedición que el inicio

que otros actores como la red mundial de ciudades magallánicas que el señor azkue ha citado antes llevan ya

una serie de conmemoraciones en toda la ruta y por otra parte que la unesco reconozca como patrimonio mundial y material la ruta magallanes

yo creo que el gobierno vasco también tendrá que coordinar con otras entidades otras instituciones el programa que vaya a realizar creo que el programa conmemorativo del quinto centenario debería de permitir

la importancia que a nivel internacional tenían los vascos en la aventura trasatlántica de la época

todo el resto de actividades de euskadi la economía la cultura y también ofrecer por qué no

sin duda también habrá que buscar la implicación de otras instituciones yo creo que es clave que la comisión europea esté implicada y también

finalmente apruebe esta iniciativa de otras ciudades de contar en su patrimonio mundial la ruta magallanes elcano hoy en día también se ha recordado aquí desgraciadamente

existe magallanes y juan sebastián elcano es un perfecto desconocido yo creo que fuera

todo el mundo cree que el que hizo la gesta fue magallanes y elcano

gracias señora presidenta egun on denoi señor lehendakari buenos días a todos incluidos

quiero hacer un saludo especial en mi primera intervención en el pleno estamos debatiendo una proposición no de ley cuyo objeto es instar al gobierno vasco para que prepare un programa de actos

elcano cuando tuvimos delante el texto propuesto por el grupo socialista decidimos no presentar enmiendas al mismo porque estábamos de acuerdo con que esa

como ya ha tenido anteriormente por otra parte y también estábamos de acuerdo con los términos expuestos por el señor azkue en su texto original

pero quiero aprovechar estos minutos que me ofrece el reglamento para mostrar la satisfacción

todos los vascos y en especial para los que somos guipuzcoanos produce recordar el viaje iniciado por magallanes y culminado por juan sebastián

efectivamente sin magallanes no hubiera nacido la expedición y sin elcano que la culminó esta no hubiera tenido la enorme repercusión internacional que ha tenido este viaje de tres años alrededor del globo terráqueo en la fachada del edificio de la diputación foral de gipuzkoa se encuentran los nombres de algunos guipuzcoanos que son recordados como personas importantes de la historia del territorio y llama la atención de que muchos

legazpi oquendo churruca y naturalmente

no es fácil hoy imaginar qué fuerzas llevaban a las personas de comienzos del siglo dieciséis a embarcar en frágiles naves y navegar hacia lo desconocido sin tener garantizado el retorno pero lo hicieron algunos fracasaron y otros marcaron

con importantes consecuencias uno de estos últimos es el que se conmemorará dentro de cuatro años el viaje

en septiembre en el puerto de sanlúcar de barrameda y retornó tres años después

y regresaron dieciocho al mando de juan sebastián elcano

en primer lugar es preciso comprender la importancia económica que tenía en aquellos momentos

navegando hacia el oeste a pesar de los esfuerzos que se habían hecho desde el primer viaje de colón sin embargo más allá de las intenciones comerciales los descubrimientos de estos expedicionarios tuvieron una trascendencia

solo citaremos dos el descubrimiento del estrecho de magallanes

es capital para el desarrollo de las comunicaciones entre los puertos sudamericanos de las costas del pacífico y el atlántico y eso

diremos que en dos mil ocho pasaron de un océano a otro por el estrecho de magallanes dos mil doscientos cincuenta y ocho buques evitando el paso por

en segundo lugar hay que pensar lo que supuso para los navegantes geógrafos y personas científicas de la época ser conscientes de que los expedicionarios

en una época en la que todavía había defensores de la teoría de que la tierra no podía ser

la humanidad de comienzos del siglo dieciséis tuvo conciencia

enormes consecuencias que tuvo para la cartografía de la época y para la ciencia en general de hecho este último descubrimiento

elcano y de la que como guipuzcoanos vascos y españoles nos orgullecemos

que desde que se celebró el cuarto centenario conmemoran cada cuatro años

en una rememoración emotiva y solemne del momento en que fue premiado con el derecho de lucir el lema

que no necesita traducción por tanto nuestro grupo está totalmente de acuerdo

terráqueo culminada por juan sebastián elcano y sus diecisiete acompañantes es un acontecimiento que debe recibir el apoyo del gobierno vasco en los términos que pedía la proposición no de ley del grupo socialista queremos resaltar también que en la justificación de esta proposición

se cita oportunamente el origen de los dieciocho supervivientes que podría tomarse como una muestra del total de los enrolados al comienzo de la expedición

así se justifica la apelación a las instancias europeas para resaltar el carácter internacional

resumiendo la posición del grupo popular se basa en tres puntos primero debe reconocerse la importancia de la proeza náutica de juan sebastián elcano

y actividades impulsadas por el gobierno vasco segundo se debe instar al gobierno vasco a coordinarse con las instituciones que también

foral de gipuzkoa y el gobierno de españa tercero

gestiones necesarias para que la conmemoración tenga el carácter de acontecimiento europeo estos tres puntos que se encontraban en la proposición no de ley original se siguen manteniendo en la transaccional por lo tanto

pnl original el señor azkue decía lo siguiente el parlamento vasco insta al gobierno vasco

con el fin de que getaria gipuzkoa y euskadi habrán una ventana de reconocimiento europeo y mundial también decía el señor azkue en su segundo punto de la pnl que el parlamento vasco

a que se compartan iniciativas con las poblaciones y territorios que tuvieron que ver con la circunnavegación y potencie las acciones que se programen eta guztiz ados nago

pero para lograr lo que pedía el señor azkue a mí me parecía mucha más fácil y sobre todo mucho más eficaz

estas acciones sin tener que contar con ningún tipo de intermediación o tutelaje y para ello qué mejor

que getaria gipuzkoa y euskadi se merecen y compartir iniciativas con las poblaciones y territorios por donde paso elcano es decir

que desde el gobierno vasco se estudiara qué pasos hay que dar para sentarse en la onu y tener un asiento y al fin y al cabo sería simplemente reanudar

del gobierno vasco ya que en mil novecientos cuarenta y cinco hace setenta años el gobierno vasco participó en la conferencia de san francisco que fue la creación de la onu

ese mismo gobierno vasco en el exilio se entrevistó y tuvo una reunión

el señor trygve lie y además le entregó un informe sobre la situación política

también para algunos medios de comunicación y quede recogido aquí en las actas el grupo euzko abertzaleak no se ha confundido en su enmienda a la totalidad y pedía lo que pedía gaurkoan gutxienez ez dira konfunditu beste egun batean agian y también hay que recordar que el gobierno vasco ha firmado varios acuerdos ya a lo largo de su historia con la unesco con unita

por último ya que estamos hablando de navegantes quiero señalar que este año es el cuatrocientos cincuenta aniversario

antes de que termine el año podría aprovechar para hacer un tipo

para ver si llegamos a algún tipo de acuerdo eta besterik gabe eskertu bai azkue jauna eta bai

miguel beñaran ordeñana argala batallón vasco españolen

kualifikatuagoa delako la condena se basa en una serie de hechos objetivos que son totalmente inconsistentes para acreditar que los recurrentes

y a ofrecer su disponibilidad para con esta hechos objetivos totalmente inconsistentes esa era la versión esa era la apreciación interpretación de adela

vicepresidenta del tribunal constitucional hoy hemos conocido la decisión de otro tribunal en este caso

rechaza que la militancia en el pp del presidente del tribunal constitucional

a su independencia algo que puede ser discutible puede ser aunque

a todos nos merecería una valoración de reproche pero avisa

entrará a enjuiciar la actuación de la jueza murillo valorará si aquel proceso en la audiencia nacional se atuvo al principio seis punto uno de la convención de derechos humanos europea que habla de un tribunal independiente e imparcial

y se posicionará ante esa valoración que subrayaba de adela asúa que consideraba totalmente inconsistentes los hechos objetivos

no se produce en las pruebas aportadas se produce en la inexistencia de hechos delictivos de hechos objetivos que

imputar esa es la conclusión más plausible que podemos hacer además de ese histórico de esos nueve procesos que he comentado que se han abierto

otegi se busca la condena

hay un interés de condena que muestra además una voluntad de persecución política una persecución inconsistente como dice asúa pero que resulta eficaz una voluntad obsesiva de que

la vulneración continuada y sistemática de su derecho a reunirse o a organizarse en torno a unas siglas legales

a llevar adelante una acción política pública transparente de manera normalizada una persecución penal no por lo que dice no por lo que hace sino por quién es por quién es quién lo dice y por quién es quién lo hace el derecho de autor en estado puro alguien pensará que otegi tiene un problema con la justicia

pensamos que es la justicia esta justicia española la que tiene un problema una irracional ceguera una manía persecutoria

y todo lo que este representa pensamos que el gobierno los sucesivos delegaron en la justicia la tarea de retirarlo de la acción política de una forma que cuadre mejor con una apariencia de estado de derecho

dicho el qué propongo analizar el por qué es decir por qué

represivo por qué pues porque pensaban que encarcelando a la persona a las personas enterraban el proyecto político que defendían porque estaban seguros de que quitando de en medio las piezas claves

le sería más favorable porque descabezando una sensibilidad política que estaba dando pasos cruciales hacia un cambio político de calado tal vez

podrían seguir gestionando de esa manera los tiempos políticos a la vieja usanza porque si nada cambiaba el panorama político tal vez

por ventajismo político puro y duro

que el que tendría que estar en la cárcel es garzón

y algo que suena sensato a la vista de la prevaricación que este juez cometió o tal vez ahora reconoce

referente de los derechos civiles y el movimiento pacifista en los estados unidos lo dijo de otra manera

está fuera de ella lamentablemente demasiadas veces esto resulta ser así hoy solicitamos de nuevo

y la solicitamos además en este parlamento como se ha dicho en más de una ocasión esta cámara no es una última de apelación por lo tanto no quiero hacer una lectura jurídica además una lectura jurídica de la cual la ultima palabra la va a tener el tribunal europeo de derechos humanos una decisión que va adoptar una decisión que

con interés y que parece además esta decisión del tribunal europeo que deja puertas abiertas a reconocer la arbitrariedad que se ha producido contra arnaldo otegi rafa diez usabiaga y los otros tres componentes del caso bateragune

lectura no jurídica como digo sino política porque hoy vamos a adoptar una decisión que es política una decisión que se sostiene sobre la mayoría de esta cámara

sobre la mayoría de la población que nos ha prestado sus votos una decisión que apunta a que esa persecución nunca debió de producirse una decisión que pretende habilitar a arnaldo otegi

a los perseguidos por sus posiciones políticas hoy vamos a tomar una decisión que incide en esta idea de respeto de todos los derechos para todas las personas en toda euskal herria una decisión que llama a la salvaguarda y protección

edo miren zabaleta horietaz aparte baita ere rafa díez usabiaga

gracias presidenta el señor

la persona que testificó ayer a favor de los jefes de eta en paris y es la persona que efectivamente de ese modo justificó

y es la persona que ha venido a defender la excarcelación de un delincuente en concreto de esta persona que tenemos aquí esta es la persona

pide eh bildu este es un documento elaborado por covite por la asociación de víctimas del terrorismo de euskadi que explica de manera resumida quién es este delincuente y cuál ha sido su trayectoria durante las últimas décadas de manera resumida y de manera

de ochocientos cincuenta y seis seres humanos ingresó en eta político militar en mil novecientos setenta y siete

proponían un proyecto que no respeta las reglas de la democracia fue condenado a seis años de prisión por secuestrar al director de la fábrica michelin

cero es el número de veces que ha condenado los asesinatos de eta cero es el número de veces que ha reconocido que matar mujeres y niños fue injusto cumplió quince meses de prisión por dar las gracias a todos los gudaris que han muerto cometiendo atentados en dos mil once

a diez años de cárcel como dirigente de organización terrorista

que ha reconocido que la violencia de eta fue innecesaria este es el delincuente señor lehendakari cuya excarcelación va a pedir usted hoy

de las últimas décadas esta es su vergonzosa aportación a la sociedad vasca y usted señor lehendakari va a pedir que este delincuente sea excarcelado alguien que durante las últimas décadas nunca ha condenado ni uno solo de los crímenes cometidos por eta

a la que vamos a asistir hoy en este parlamento este es el delincuente por lo tanto cuya excarcelación va a pedir nada menos que el lehendakari en la sesión de hoy una persona cuya trayectoria fundamental ha sido la de defender criminales de eta y por eso está en la cárcel con sentencia firme con sentencia de los tribunales españoles con sentencia avalada por el tribunal constitucional y el tribunal supremo una vergüenza mayúscula que ustedes otra vez

a los amigos de eta para pedir la excarcelación de este delincuente durante las últimas décadas ha habido decenas de personas

y del partido socialista de euskadi que han sido perseguidos por estas personas por los amigos de los criminales y por eta misma

esas son las personas que hay que poner en valor decenas y decenas centenares de personas cargos públicos y personas anónimas que han estado defendiendo

la excarcelación de un delincuente cuya trayectoria delictiva la conocemos todos por cierto si tienen usted algún dato que aportar a la wikipedia pueden hacerlo quizás alguna de sus fechorías que no está recogidas en wikipedia pueden ser

conocen de primera mano algunas de esas fechorías una vergüenza señor lehendakari esta es la persona cuya excarcelación va a pedir hoy usted y este es el libro que recoge los más de ochocientos asesinatos cometidos por eta estos sí que fueron perseguidos por eta

y por todos esos dirigentes políticos que lo que hicieron fue defender las ideas criminales de eta y justificar sus asesinatos estos sí que fueron perseguidos por eta estos sí que fueron perseguidos por arnaldo otegi

de defenderse estos sí que no tuvieron un juicio justo qué les décimos a estas personas o a sus familiares señor lehendakari cuando ustedes hoy

de este delincuente estos sí que fueron perseguidos por eta la banda criminal por arnaldo otegi

siguen sin condenar los asesinatos por eta una vergüenza mayúscula afortunadamente

está en prisión afortunadamente rafa díez está en prisión es justo que estén en prisión teniendo en cuenta

teniendo en cuenta su trayectoria una vergüenza por lo tanto lo que ustedes

una vergüenza que tengamos un lehendakari que va a pedir la excarcelación de un delincuente eskerrik asko maneiro jauna

bien aunque ningún sistema político es perfecto

creemos que es el poder ejecutivo el que tiene que gobernar el poder legislativo el que tiene que hacer las leyes y controlar al gobierno y que es el poder judicial el que tiene que aplicar las leyes y velar por su cumplimiento por lo tanto procuramos ser respetuosos con las sentencias de jueces y tribunales y lo hacemos en todos los casos cuando las resoluciones son de nuestro agrado cuando nos gustan algo menos y cuando no las compartimos y hay muchos casos de estos supongo que la totalidad de los presentes en esta cámara considera que ejerce sus responsabilidades parlamentarias con absoluto rigor y profesionalidad pues tenemos que acostumbrarnos a pensar que también los jueces procuran hacer su trabajo del mismo modo

con su contenido para eso está la capacidad de criticarla razonablemente y de recurrirlas hasta la última instancia

fueron condenados por la audiencia nacional bajo la acusación de recrear las estructuras de una formación política que había sido declarada ilegal por sus vinculaciones con la organización terrorista eta una decisión por cierto esta última que fue plenamente validada por el tribunal de derechos humanos

la condena de la audiencia nacional de dos mil once fue ratificada un año después

rechazó el recurso de amparo también con una ajustada mayoría

hoy hemos conocido precisamente hoy en el día en que debatimos esta moción

contra el dirigente de batasuna se respetaron o no los principios recogidos en el convenio europeo de derechos humanos

se han rechazado tres de los argumentos de la defensa y sobre el siguiente se ha aplazado la decisión hasta que el gobierno de españa presente alegaciones sobre la actuación de la audiencia nacional

de la misma forma que aceptamos su resolución sobre la aplicación de la ley de partidos a las formaciones ilegalizadas de la izquierda abertzale y asumimos también

y lo hacemos por convicción porque creemos que no es tarea de este parlamento ni de ningún otro enjuiciar a quienes enjuician ni mucho menos suplir a jueces y tribunales

esta es la postura que dejamos clara en nuestra enmienda y a la que nos vamos a atener siempre no se trata como he señalado de que no se puedan criticar las resoluciones judiciales faltaría más lo que décimos en nuestra enmienda es que las críticas que los representantes institucionales pueden hacer a las declaraciones de los tribunales

y la independencia judicial por otro lado se insta a los gobiernos central y vasco a que de acuerdo con sus respectivas competencias y actuando coordinadamente promuevan actuaciones que favorezcan la reinserción social de los presos condenados por delitos de terrorismo

y asuman públicamente su responsabilidad reconociendo ante las víctimas

la injusticia del daño que causaron sus acciones y finalmente se solicita a los presos condenados en firme por esos delitos a reconocer la legalidad penitenciaria al tiempo que se recuerda el derecho que tienen q recurrir las sentencias que no son inapelables es indudable

tiene trascendencia política como la tuvo la ilegalización de batasuna

que responde exclusivamente a motivaciones políticas de seguir la argumentación que expone bildu en su propia justificación de la moción la condena de arnaldo otegi habría estado totalmente justificada en dos mil cuatro o en dos mil cinco pero no en dos mil nueve

comenzó a girar hacia la política sin pistolas pues creemos que no

a que había una ley que prohibía dar continuidad a formaciones que habían sido ilegalizadas y disueltas por sus vínculos con unaorganización terrorista y tres instancias judiciales tres juzgaron que los condenados vulneraron esa prohibición y se podrá estar de acuerdo o no con la ley de partidos cuya aplicación a batasuna fue considerada necesaria y plenamente ajustada al convenio de derechos humanos por el tribunal de estrasburgo

y se puede discrepar con las sentencias de la audiencia nacional del tribunal supremo y del tribunal constitucional sobre el caso bateragune que como se ha recordado aquí se decidió por siete votos a favor y cinco en contra como usted ha recordado

quiero recordar que fue una magistrada propuesta por este partido por el partido socialista de euskadi al tribunal constitucional

del mismo pero de ahí de esa discrepancia en las decisiones judiciales entre los diversos miembros que componen los tribunales a las conclusiones de reducir todo a razones de motivaciones políticas

puedo aceptarle que el hecho de que en nuestro país llevemos viviendo cuatro años sin atentados ni amenazas

hace que a sectores importantes de la sociedad les choqué la permanencia

pero eso es otra cuestión distinta de la que estamos tratando aquí porque entrando en motivaciones políticas también podríamos hablar de por qué euskal herria bildu está centrando toda su campaña en la excarcelación del señor otegi que se producirá en cualquier modo dentro de cinco meses

en la enmienda con la que secundan su iniciativa tampoco sería

podría haber salido de prisión mucho antes de haberse acogido a las posibilidades que ofrece actualmente la legislación penitenciaria y ha tenido y sigue teniendo

que tienen que recorrer para acogerse a las medidas de reinserción y acortar su condena no ha querido ejercerlo ese derecho

pero recordemos que hay presos de eta condenados a penas muchísimos más graves por asesinatos que sí han recorrido ese camino

la moción que nos presenta bildu y evidentemente vamos a votar la enmienda que hemos presentado eskerrik asko pastor jauna zuzenketarik aurkeztu ez duen taldea

gracias señora presidenta señor arzuaga usted con ese tono plano

intervenciones ese tono de conferenciante sin embargo no ha conseguido tapar en absoluto la falsedad de sus afirmaciones porque toda su conferencia

como también se ha dicho es el inicio de la campaña electoral de la siguiente campaña electoral para la bancada de bildu en la figura del enaltecimiento

de absolutas falsedades precisamente además lo que hace

su intención es falsear el pasado contar un pasado que nada tiene que ver con lo que sucedió y falsear

las resoluciones judiciales también

de la democracia española y por lo tanto de sus tres poderes pues es absolutamente baja es verdad no es nuevo que se pida en esta cámara

hace poco más de un año el veintitrés de octubre del año pasado

estábamos pidiendo o hace dos años parecido lo mismo en el dos mil trece

es nuevo que ustedes pretendan convertir esta cámara en un tribunal de apelaciones y lo hacen

esgrimiendo argumentos políticos porque los jurídicos los han esgrimido en los tribunales de justicia que es donde reside el poder judicial y como argumentos eran insuficientes como esos argumentos no producen las resoluciones que ustedes desean que se produzcan no las justas las que ustedes desean que se produzcan pues nos lo traen aquí para judicializar este parlamento y yo ya sé que

asumir determinados principios democráticos les cuesta pero se lo han dicho aquí la separación de poderes y la independencia judicial son premisas indiscutibles en un estado de derecho y en este estado de derecho a quien corresponde dictar las resoluciones judiciales es

a los jueces y no a este parlamento son los jueces los que deciden las razones por las cuales una persona está o no está en la cárcel o por las cuales una persona puede permanecer o puede salir de la cárcel no es este parlamento el que lo va a decidir

quisieran porque gracias a la ayuda del partido nacionalista vasco si fuera así si decidiese este parlamento

estaría en la calle pero son las razones jurídicas fundamentadas jurídicamente las que

aunque ustedes digan que no las que dan lugar a las resoluciones judiciales y claro que una resolución judicial en democracia es criticable por supuesto

no se puede hacer que es lo que ustedes hacen es poner en solfa la calidad de ese poder judicial eso sí cuando las sentencias

y las sentencias que les son favorables y también se toman por tres a dos

realmente están de acuerdo con sus postulados esas sí y es que en democracia cuando un tribunal está compuesto de forma paritaria

es la que acaba diciendo cuál es el sentido de la sentencia y las sentencias hay que criticarlas con argumentos mínimamente jurídicos

políticos que es lo que se ha hecho aquí el señor otegi como se ha dicho aquí fue condenado a seis años y medio de prisión por un delito básico de integración en organización terrorista

a través de ese proceso que se ha llamado bateragune y

le han hecho aquí quienes me han antecedido en el uso de la palabra hay que recordarle que ese tribunal de derechos humanos a quien usted

y que hoy mismo la ha enarbolado aquí ese mismo tribunal el mismo fue el que dijo

absolutamente justificada el mismo pero claro lo que le digo las resoluciones judiciales solo

cuando nos satisfacen a nuestros postulados y ustedes tratan de ensalzar la figura del señor

y alguien que no condenó que no ha condenado nunca ni tan siquiera ha reprochado la actividad criminal de eta pero es que no la haya

algunos tiene también un pasado de participar en la banda terrorista eta

señala que la admirable y única organización que durante los últimos treinta cuarenta años ha liderado un movimiento por la libertad ha sido eta

al miembro de este parlamento fernando buesa con quien compartía debates no fue capaz de alzar la voz no dijo nada hasta la semana anterior había estado debatiendo con él

su asesinato es más lejos de condenarlo lo único que hizo fue criticar la ruptura del pacto de gobierno que mantenía con el partido nacionalista vasco y señalar

y que las decisiones políticas no se podían tomar al albur de reacciones viscerales o sea condenar un atentado y oponerse a un atentado es una reacción a la que no se puede sucumbir también señaló en ese momento

nadie tenía más autoridad moral en este país que la izquierda abertzale los que más habían contribuido por la utilización de vías democráticas parece una sátira como su intervención anterior señor una broma de mal gusto que provocaría la sonrisa al escuchar esa broma si no estuviéramos hablando de algo tan trágico

con relación a las víctimas de eta les ha pedido disculpas pero no por los atentados les ha pedido por si alguna de sus declaraciones les hubiera podido ofender ese

y ese es quienes ustedes intentan convertir en referente político

por querer volver a crear batasuna brazo político de eta

en el dos mil catorce el tribunal constitucional rechaza la posibilidad de conceder a los condenados por el llamado caso

por lo tanto decidía mantener en prisión a la espera de resolución ante esta resolución es verdad que el propio

y yo le pregunté en esta cámara por esas declaraciones porque como digo las razones que fundamentan la estancia en prisión

es intentar reconstruir un partido ilegalizado que había sido considerado como de la banda terrorista eta es verdad que hubo más declaraciones como que todo ese proceso era un sin sentido que estaba basado en indicios y suposiciones

que fueran indicios o suposiciones los que habían llevado a la condena señalaba que se habían respetado las exigencias constitucionales para considerar enervada la presunción de inocencia

y señalaba literalmente que no es el hecho de compartir los objetivos secesionistas de eta lo concluyente para impedir que actuaban bajo la dirección de la organización terrorista sino que lo ha sido

su actuación era del todo coincidente en lo relativo a la consecución de unos objetivos políticos y también en cuanto al uso de los medios violentos

que es lo que define a las organizaciones terroristas

fuera de la cárcel podría hacer más por la paz que dentro al margen como digo del dudoso trabajo por la paz que pueda hacer el señor otegi

en las resoluciones judiciales solo se tienen que tener en cuenta criterios jurídicos estrictamente jurídicos

decidir sobre la duración o posible reducción de una condena y quienes han tenido cargos de responsabilidad se les debería de exigir este criterio voy acabando ya porque estoy finalizando el tiempo ustedes lo que quieren

una justicia que les dé la razón a ustedes y que solo es justicia cuando se la da a ustedes y que si no

si no no es justicia y no existe la democracia y yo quiero finalizar con una cosa en esta campaña que ustedes están haciendo con la iconografía de la camiseta del número y luego podremos hablar más de ello intentando compararlo

persecución política los de esa bancada los de esa bancada que no podíamos defender nuestras ideas

para dar respuesta a alguna de las cosas que se han dicho aquí el señor maneiro dice que es una vergüenza mayúscula solicitar la excarcelación

eso precisamente si era lo que demandaba adela asúa con esa declaración de que los hechos que le habían

inconsistentes ella también estará en ese ámbito de vergüenza mayúscula que usted quiere establecer parece ser que si no se dicen palabras no decir palabras ya no es el problema de lo que se dice sino lo que no se dice

yo lo que digo será motivo en todo caso de debate político del debate de las ideas pero jamás de una

penal usted habla en su enmienda de una solicitud

los esfuerzos a qué se refiere a redoblar en recursos policiales en redoblar

la represión a este país como si no hubiese tenido suficiente su posición irresponsable nuevamente

la señora llanos nos dice que no protestamos cuando las sentencias nos son favorables me imagino que cuando en este tipo de procesos se obtiene una resolución de absolución de archivo o de declaración de inocencia

favorables pero para nosotros cualquier proceso que se ha sostenido

vulneración de derechos civiles y políticos básicos para nosotros ese proceso es desfavorable con su mero arranque con su mero inicio con las detenciones con los actos de investigación con las declaraciones

en todos esos casos se nos está dando una sentencia desfavorable

de la propia redacción de la sentencia y de la condena que en la mayoría de los casos viene aparejada el señor pastor me dice que parece que se nos ha olvidado algo cuando traíamos solamente

tal vez es el caso que mejor simboliza lo que ha sucedido en este país pero no se nos olvida nada ni se nos olvida rafa díez usabiaga

ni se nos olvida todavía todas esas personas que están en prisión por haber ejercido derechos civiles y políticos de los sumarios del dieciocho barra noventa y ocho de gestoras de askatasuna que creo que deberían de venir también reflejados en la decisión que vamos a adoptar hoy no se nos olvida nada en su enmienda introduce que los presos condenados por delitos de terrorismo deben

romper con su pasado para obtener ciertos beneficios claro un pasado inmediato el del señor arnaldo otegi que

inicia una maniobra política de calado en este país para que todos los proyectos políticos se puedan defender por vías democráticas también a eso debe de

de las ideas que le llevaron a prisión cómo puede colaborar con las autoridades para detectar

a otros miembros de eta cómo puede reconocer el daño causado por sus declaraciones creo que lo hace creo que lo hace pero cuál es el causado más allá de ello me dice que es un juicio que tiene dimensión política pero que no surge de un impulso político y yo le digo

que una injusticia hecha al individuo es una amenaza hecha contra toda la sociedad es cierto que ha habido otras

cernido muchas amenazas pero son ustedes los que nos suelen dar lecciones de no equiparar o de no comparar injusticias vamos al caso vamos al caso el caso de arnaldo otegi solo se puede entender en términos de

vamos a perfeccionar el proyecto perfeccionar el proyecto era sacar la herramienta de la ley de partidos políticos y la ley de partidos

y creo que era el veintiséis de agosto veintiséis de agosto sus señorías tuvieron sesión plenaria en el congreso porque ya el gobierno iba

con la ley en la mano ante el tribunal constitucional ese mismo día arranca el juez garzón con sus autos ese mismo día

el más efectivo en la tarea contraterrorista y yo termino con

ha conocido antes y después y se ha referido al señor garzón también

hoy a quien le quiera escuchar dice

fue una cabezonería de alfredo cabezonería de alfredo evidentemente

y después el señor garzón habla de la necesidad o de la idoneidad de

pues bueno si esa es la independencia judicial que ha habido si se quiere negar una y otra vez que aquí hubo impulso político

cuando eta rompe el alto el fuego el partido socialista obrero español responsabiliza a alguien no ya a quien ha cometido

necesita hacer algo y se encuentra con el proceso bateragune pero es que la realidad ha desmentido la realidad demuestra que quienes

estaban propiciando un escenario radicalmente distinto al que conocieron y esa es la realidad yo creo que se acerca muchísimo más a la verdad esto que cuento que no la otra historia

permanentemente hay que justificar decisiones

y rafa díez usabiaga están condenados por sentencia de la audiencia nacional

y el tribunal constitucional y por ello están en prisión afortunadamente nos parece bien nos alegramos de ello pensamos que es justo están en la cárcel por delitos cometidos delitos que están perfectamente tipificados

y vista toda su trayectoria de décadas efectivamente nos reafirmamos en que es justo que una persona con esta trayectoria esté donde hoy está es justo y lo que es una vergüenza mayúscula insisto es que el partido nacionalista vasco y eh bildu

de este delincuente y que tengamos un lehendakari que pida la excarcelación de un delincuente se habla de manera reiterada de motivaciones políticas de impulso político cuál fue la motivación política durante largos años

la motivación política el trabajo político el impulso político

acompañar a eta justificar a eta permitir que eta existiera alargar la vida de eta este fue

y consecuencia de ese trabajo ha habido más de ochocientos asesinatos del país decenas centenares de personas que fueron asesinadas como consecuencia de ese trabajo realizado

esta es la realidad y esto es lo que cabe decirse ni unos solo de esos asesinatos fue condenado por

no fue condenado sino que los justificó de diversas formas y con distintas declaraciones esa es la realidad y como consecuencia de ello

de que trabajó a favor de eta por lo tanto nos alegramos de que estas personas

para que todos los proyectos políticos pudieran defenderse no perdone los proyectos políticos democráticos podían perfectamente defenderse

con bastantes dificultades en el caso de los proyectos políticos del partido popular y del partido socialista que tenían que ser defendidos bajo protección policial como consecuencia de las acciones criminales de eta que otegi

esta es la realidad por lo tanto los proyectos políticos podían defenderse salvo los proyectos políticos defendidos por el partido popular y por el partido socialista

la realidad señor lehendakari usted considera un referente social o un referente político

considera usted un referente social sindical o político la trayectoria del señor rafa díez usabiaga porque esto es lo que ha venido a plantear el señor egibar considera qué estos son referentes

los ciudadanos anónimos que durante años se enfrentaron a eta las personas que trataron de defender sus ideas con la voz y con la palabra esos son nuestros referentes nuestros referentes nunca podían haber sido quienes justificaron a eta nunca

en la vida y esto es lo que su portavoz ha dicho otra vez hoy en esta cámara no solamente por lo tanto no criticó ni condenó las acciones criminales de eta sino que las justificó esto fue lo que dijo otegi tras el asesinato de josé luis lópez de lacalle esto fue lo que dijo

del año dos mil con esto eta pone sobre la mesa el papel de los medios de comunicación y de determinados profesionales que plantean una estrategia

y esta persona que dijo eso en aquel momento ustedes piden su excarcelación como digo una vergüenza mayúscula y efectivamente sí nuestra enmienda lo que

a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado y al conjunto de las instituciones del estado evidentemente a redoblar esfuerzos al objeto de detener a todos los miembros o colaboradores de la banda terrorista que a día de hoy siguen
efectivamente esto es lo que pedimos que todos los delincuentes puedan ser detenidos y que se haga justicia cuanto antes eskerrik asko maneiro jauna

gracias presidenta mire señor arzuaga yo no les niego ni a ustedes ni a nadie la capacidad de criticar las decisiones judiciales

en una especie de última instancia judicial para pedir lo que no les ha dado la justicia porque eso no es lo que se hace en un estado de derecho me preguntaba usted que más tiene que hacer arnaldo otegi que de lo que hizo en aquella declaración

exactamente lo mismo que han hecho unos cuantos etarras de la vía nanclares que se han acogido a los beneficios penitenciarios y que están ahora mismo disfrutando de ellos y yo quiero creerme de verdad cuando ustedes dicen que quieren hacer una autocrítica y una revisión de su pasado pero se quedan en esa declaración porque hace cuatro días cuando ustedes tuvieron la oportunidad de apoyar un texto en el que solamente recordábamos que en este país había habido asesinatos por pensar diferente se negaron siquiera a que esa palabra esa frase esa expresión apareciese

de la sinceridad o de las posibilidades reales no sé cuál es el problema que tienen ustedes para hacer de verdad esa autocrítica y esa revisión crítica de lo que ha pasado en este país

porque a la justicia se la puede criticar y en aquella época hubo otros dirigentes políticos también procesados quiero recordar al lehendakari ibarretxe

de la izquierda abertzale para avanzar en el fin del terrorismo

a los tribunales de justicia aunque no compartíamos la admisión a trámite de aquella querella que sí tenía intencionalidad política y no montamos ningún espectáculo público como otros hicieron por cierto lo que hicimos fue defender con gallardía lo que habíamos hecho ejercitar nuestro derecho a la defensa y afortunadamente se impuso

y el sentido común y no hicimos nada más y esa misma actuación que nosotros hemos practicado cuando nos ha tocado es la que les pedimos a ustedes que ejerciten exactamente igual mire señor egibar yo no tenía intención alguna de referirme al partido nacionalista vasco en esta ocasión

como suele ser habitual a contarnos la teoría de la conspiración mundial y quiero recordarle que ustedes basaron toda su estrategia de oposición a las medidas legislativas que hacía el gobierno de entonces o los gobiernos

toda su estrategia estaba basada en que vulneraba el convenio de derechos humanos europeo

validó y dijo que era oportuna la aprobación de la ley de partidos de eso usted se olvida

en su argumentación se olvidan del asunto y creo que debieran de ser un poco más prudentes a la hora de realizar algunas

que corresponde evidentemente siempre para ponerse en la fase de la víctima correspondiente porque no es así sean ustedes un poco serios con los temas

un poco de su ideología o de esa intención de quedar siempre bien con todo el mundo a menudo con estos señores

rédito político lo contrario y hagan las cosas con seriedad y cuando no se les da la razón reconozcan que no la tienen y cuando la ley de partidos a la que ustedes han criticado hasta la saciedad resulta que es avalada por un tribunal nada menos que el de derechos humanos tenga la gallardía de salir y reconocerlo porque estoy por oírle una sola vez reconocer que eso pasó
como pasó y no como usted quería que pasase eskerrik asko pastor jauna

gracias de nuevo señora presidenta voy a comenzar precisamente por donde ha finalizado el señor pastor efectivamente

siempre siempre se ha mostrado en contra de la ley de partidos que devino como una ley necesaria y con una ley que por mucho que ustedes dijeran y lo dijeran muy alto

no vulneraba no vulneraba esa libertad de reunión y asociación no la propia sentencia decía

la defensa de ideas o doctrinas que cuestionan el marco constitucional sino a conciliar

con el respeto a los derechos humanos y la protección de la democracia y desde instancias judiciales europeas se vino a reconocer

no era únicamente el comando que daba el tiro en la nuca o el comando que ponía la bomba no que existía un brazo político un brazo político consorciado con la banda terrorista eta

esa estrategia de eta y eso lo dijeron las instancias europeas pero ustedes quieren que el contexto político y eso es ir en contra de la separación de poderes determinen cuáles tienen que ser las actuaciones que tienen que realizar el resto de los poderes ustedes no quieren que haya detenciones porque

hay que juzgarle y si existen pruebas suficientes para considerar que es culpable meterlo en la cárcel y si quiere salir de la cárcel

cumplir con los requisitos que están legalmente establecidos y que nos hemos dado entre todos para poder salir de la cárcel pero nadie puede en virtud de un contexto político o de una idea política o de una presión política saltarse la ley qué es lo que ustedes quieren

justicia de aquí de jueces de aquí esos mismos jueces que tenían que ir con escolta aquí aquí

supongo o es que ese está contaminado políticamente

son válidas mire se lo he dicho antes es que ustedes

en las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado cometen

y sacan las declaraciones con tortura los jueces de instrucción cometen

las audiencias también el tribunal supremo también todo todo está contaminado todo todas todas en todas las resoluciones

ustedes son los que fijan los parámetros de lo que es la democracia y de lo que es la justicia y todo aquel que no se somete a esos parámetros no es demócrata

y desde luego no imparte justicia y antes no podíamos hacer ni política porque mire ustedes

si cuando en el concierto le copiaron cuando mandela llevaba el numerito ustedes lo copiaron y ponían el número de preso de otegi y ustedes lo han intentado

una y otra vez lo que no cuentan es que el partido de mandela les dio con la puerta en las narices cuando después del atentado de la tmenos cuatro no dijeron ni mu y

y le pareció lo que usted ha dicho esas otras injusticias que ha habido aquí que hay que tener valor para llamar injusticias

a los tiros en la nuca a las bombas a la presión a la que han tenido sometido a toda la sociedad vasca eso son las injusticias les dieron con la puerta

ustedes intentan hacer ver que mandela si viviera

no se equivoquen no se equivoquen mandela no estaría de su lado

y aquí los negros que hemos estado sometidos al apartheid somos esa bancada y ustedes eran los blancos que jaleaban